han consolidado el actual orden de las cosas mentiras que al más puro estilo

dentro del orden natural de las cosas han pasado a ser verdades irrefutables

el problema es la ceguera que nos han inoculado ese virus que nos hace aceptar la injusticia y la inmoralidad capitalista como el mejor de los mundos posibles

ni con nuestras mentes ni con nuestros actos por ello hemos traído este debate hoy a esta cámara para contribuir también desde aquí a que la ciudadanía vasca

es necesario explicar que la actual situación no es solo la consecuencia de una crisis financiera sino que fundamentalmente es un plan trazado desarrollado

y sin consecuencias hasta hoy para los perpetradores de estas acciones criminales egoera eta errealitatea salatzea beharrezkoa dela uste dugu beharrezkoa da azaltzea jendarteari nortzuk diren gaur egun bizi dugun krisiaren errudunak los datos no engañan el mundo en el que

y de las estructuras generadas por el banco mundial y el fondo monetario internacional más bien todo lo contrario el desarrollismo intensivo al que nos vimos obligados en europa tras la segundo guerra mundial sirvió para expandir el control económico financiero y militar de estados unidos

y que contraponía el modelo económico capitalista ese expansionismo capitalista se ligó al de las empresas y las entidades financieras norteamericanas y así controlaron y parasitaron todos los espacios que habían quedado libres tras la segundo guerra mundial desde europa

oriente medio y próximo oriente el camino de tal control se tenía que realizar mediante estructuras económicas y militares que favoreciesen

basado en la dependencia económico financiera y no tanto en el sistema político

devastados por la guerra valían desde las dictaduras de derechas hasta sistemas democráticos representativos la diferencia de europa respecto al resto del mundo fue

esto fue avalado por las élites económicas y políticas contrarias al socialismo la reconstrucción de aquella europa se realiza de la misma manera que ahora

grandes prestamos para paliar la deuda pública de postguerra

estados títeres cercanos a los intereses del nuevo orden mundial que avalan y aceptan el orden de las cosas en una lucha permanente contra el desarrollo de las fuerzas de izquierdas que apostaban

económico y de manipulación hasta nuestros días sin olvidar la creación en mil novecientos cuarenta y nueve

mediante la instalación de cientos de bases militares de los estados unidos por todo el mundo el objetivo es evidente controlar y presionar a los estados tanto en lo económico como en lo político bajo la amenaza militar nada nuevo un nuevo imperio estaba poniendo las estructuras para su desarrollo

desde puestos de responsabilidad no lo quiso ver al igual que quien no lo quiere ver ahora

ni necios son estómagos agradecidos que sirven a los intereses del capital y de su amo bi erakundeen agintean egon diren

aurkakoak por el contrario es posible que algunos de ustedes nos digan que las funciones de estas dos instituciones

y generar mediante la financiación de proyectos al desarrollo económico del local o que pueden ser transformadas también nos pueden llegar a decir pues no la realidad y la historia de las actuaciones de dichas instituciones

dicha realidad nos muestra que mediante los prestamos billonarios concedidos se buscaba la privatización y explotación de los recursos naturales de países y pueblos quienes realmente se han beneficiado de dicho dinero

han privatizado explotado y privatizado los recursos energéticos y esa es la única realidad que ha existido

mediante la deuda se ha privatizado los servicios sociales y los recursos naturales mediante esa deuda odiosa se han eliminado los derechos sociales y laborales mediante esa deuda criminal pueblos esclavizados por los intereses y por la dependencia económica no les suena nada ni el aumento real de la pobreza mundial

la casualidad no existe existen políticas creadas por parte del fondo monetario internacional y del banco mundial con el fin de que estados unidos y sus empresas mantengan su posición de imperio mundial quien niegue esta realidad

se convierte directamente en colaborador necesario del régimen

son quienes han apoyado y financiado a dictaduras para mantener sus intereses

y mantener y reforzar su poder geoestratégico son quienes han asesinado directamente o financiado golpes de estado a presidentes democráticamente elegidos

económico financiera impuesta por el fondo monetario internacional y el banco mundial recordemos el golpe de estado contra salvador allende en chile jacobo árbenz en guatemala mosarej en irán la de goulad hasta la de los sandinistas en los años ochenta recordemos a omar torrijos presidente panameño que pretendía

también fue asesinado recordemos el golpe de estado contra hugo chávez gestionado y financiado también por las empresas

recordemos el apoyo financiero y financiación militar a la dictadura de abiarimana en ruanda hasta el año mil novecientos noventa y dos con la masacre de entre medio millón y un millón de personas y encima tras el fin del genocidio el banco mundial y el fondo monetario internacional exigieron

el pago íntegro de la deuda contraída por el régimen genocida anterior sostuvieron las peores dictaduras hasta su derrocamiento recordemos suharto en indonesia desde mil novecientos sesenta y cinco

a marcos en filipinas desde mil novecientos setenta y dos etcétera etcétera siguen pensando que es una casualidad y que no existen responsables datuok esanguratsuak dira lehen mailako kriminalek egindako ekintza kriminalak

la riqueza hoy en europa se está acumulando en las élites financieras el poder financiero es hoy quien mantiene el estado actual de las cosas a través de la deuda

no hay salida posible europa vive hoy lo que los estados que se llamaron en vías de desarrollo y los estados creados tras la caída de la urss soportaron durante los años noventa endeudamientos

ese es el modelo no es nuevo y el sur de europa lo estamos padeciendo ya en la actualidad

no solo se asesina y se acometen genocidios mediante la utilización de armas los genocidios de pueblos enteros y de la clase trabajadora se hacen desde despachos en definitiva desde las instituciones financieras y económicas mundiales ustedes y nosotros y nosotras debemos combatirlas para poder sobrevivir y para poder dar un futuro

a las futuras generaciones de lo contrario seremos cómplices también y asumiremos nuestro papel de esclavos y esclavas

de rosa luxemburgo quién no se mueve no siente las cadenas

gracias presidenta buenos días señorías efectivamente voy a coincidir en varias cosas con el señor munain que no le veo pero bueno

y del banco mundial organismos cuya labor viene siendo denostada y con razón porque es

respuestas multilaterales a la actual crisis global y probablemente eso se deba entre otras muchas cosas a un cierto déficit desde su concepción

no es por casualidad coincide también en que ambas instituciones financieras internacionales surgieran de la conferencia bretton woods en julio de mil novecientos cuarenta y cuatro impulsada por roosevelt con el objeto de garantizar

y crear un orden económico internacional capitalista por supuesto obviamente

para la construcción la reconstrucción de una europa devastada por la guerra y también para dotar de recursos probablemente seguro insuficientes a países en vías de desarrollo pero desde luego desde los años mil novecientos setenta mil novecientos ochenta y quizá para concretar más

en la que el precio se multiplica por cuatro y la crisis de la deuda de mil novecientos ochenta y dos de la que se deriva aquella aberrante situación de la que en los denominados países del tercer mundo

la concesión de esos créditos de los recursos quedó condicionada a la previa implantación de duros programas de ajuste estructural de severas medidas de reducción del gasto público a medidas y liberalización financiera y comercial a privatizaciones etcétera efectivamente

estamos viviendo una política que como aquella no provoca otra cosa que la paralización del crecimiento económico el aumento de las desigualdades sociales

todas esas conquistas señorías por las que tanto hemos luchado que tanto esfuerzo nos han constado conseguir y que se están disolviendo delante de nuestras narices delante de nuestros ojos como un azucarillo en el agua

dónde y cuándo hemos dejado esos principios democráticos de solidaridad de sostenibilidad de cooperación esos principios inspiradores de las sociedades decentes dónde cuándo eso es lo que tenemos que pensar efectivamente

son causa y consecuencia previsibles por otro lado de la aplicación desconsiderada de esas políticas neoliberales de esas políticas antisociales

parece no sé si sería la palabra correcta pero sí parece por lo menos

fiar la solución y el resarcimiento de los perjuicios provocados por la actuación interesada de estos organismos que están sujetos al dictado de estados que pretenden defender sus propios y exclusivos intereses y mantener su estatus

al derecho penal internacional pero lo que desde luego sí está claro

como el banco mundial no cumplen ni de lejos con los objetivos a los que debieran

recursos necesarios para un desarrollo sostenible e instaurar un sistema económico mundial estable seguro y sobre todo justo la interdependencia entre las economías nacionales y el sistema económico mundial exige un enfoque universal y una cooperación internacional fuerte que garantice la utilización optima de los recursos financieros implementando normas de ámbito

de manera que también corresponde adoptar medidas urgentes para paliar y para reducir las consecuencias fundamentalmente sociales que la crisis ha producido en el empleo

todos esos objetivos recogidos en la declaración

como en todo hay personas que dicen que esto puede ser

lo que sí corresponde también desde luego es proteger a los consumidores reprimir eficazmente los delitos financieros y sobre todo lo que corresponde a los gobiernos de los países desarrollados es cumplir ya con su compromiso con los países en vías de desarrollo para poder combatir esos problemas económicos internos eliminar la pobreza

alcanzar tasas de crecimiento dignas eso es lo que toca y en definitiva para ello a nuestro juicio es necesario transformar radicalmente y democratizar las instituciones financieras internacionales garantizando la visibilidad de los estados eliminando derechos de veto

y que el fin sea conseguir una sociedad más justa más libre y más

hemos firmado la enmienda de transacción que sometemos al criterio de esta cámara y para la que os pedimos el voto afirmativo de los grupos que textualmente dice y yo creo que es impecable y que por lo tanto debiera concitar el apoyo

exige la transformación de las instituciones financieras internacionales

y les reclama que a la hora de diseñar las condiciones económicas y ajustes estructurales tengan siempre en cuenta que la economía debe estar al servicio del progreso social y no supeditadas al interés de los mercados el parlamento vasco

una normativa internacional que regule los mercados financieros y los productos especulativos ya

durante la década pasada ha provocado la crisis financiera

a la economía real y a los niveles de bienestar de la ciudadanía el parlamento vasco insta además a todas las instituciones implicadas y especialmente al fondo monetario internacional

mundial a que apliquen como criterio básico del diseño de todas sus políticas el respeto a la dignidad humana y a la justicia social y a que dirijan todos sus recursos al logro de los objetivos de desarrollo propugnados por la onu señorías

un paso adelante hacia una sociedad más decente y más justa habremos conseguido algo gracias eskerrik asko gallastegui andrea

egunkari batetan irakurrita que la unesco quiere que la mitad del mundo sea gay en veinte años claro eso tiene que ser algo así como mediatizar y teledirigir las preferencias sexuales de la gente eso sin duda también merece

por decir tonterías o por vender libros de sumisión

al año aunque se espera que vaya a terminar el año con un cincuenta por ciento de inflación

aunque tiene las tiendas desabastecidas de productos básicos ha creado

ante un viceministerio de la suprema felicidad social

hay que plegarse yo sin más también a los proponentes les pediría que voten a favor de la enmienda que por lo menos tiene buena voluntad y es razonable no sé si será efectiva que hemos transado con el partido socialista

considera al banco mundial y al fondo monetario internacional

representativas de un capitalismo criminal y caníbal según su argumentación el banco mundial y el fondo monetario internacional en colaboración con el banco central europeo y con la unión europea es decir

están destruyendo el estado del bienestar en toda europa para conseguir este objetivo de subyugar a los estados con la implantación de medidas que según eh bildu

en contra de los intereses legítimos de la sociedad en este sentido afirman que estas instituciones han colocado

gestionando los gobiernos y utilizando la especulación

a la clase trabajadora a la esclavitud y a partir de ahí los acusa

a millónes de personas y propone suprimirlos condenarlos y no sé si ejecutarlos al amanecer seguramente también y también a nosotros

en fin este es un poco el resumen de lo que propone eh bildu en un parlamento que supuestamente quiere ser serio y que quiere aportar algo de sentido común para mejorar

en fin esta es la propuesta estos son los términos que plantea eh bildu esto es lo que básicamente propone más allá de que sean propuestas imposibles e inverosímiles más allá de lo que ya se ha dicho hasta ahora

populista demagogo antidemocrático y antipolítico por lo tanto este discurso de eh bildu es enormemente peligroso

de los ciudadanos europeos y del mundo y es un discurso ciertamente a erradicar nosotros no proponemos ejecutar a nadie como básicamente proponen ellos lo que nosotros básicamente defendemos es la política la democracia e impulsar desde los parlamentos desde las instituciones democráticas los cambios que sean necesarios

obviamente nosotros estamos de acuerdo con las enmiendas planteadas por el grupo socialista y por el grupo nacionalista vascos plantear

en particular del fondo monetario internacional y del banco mundial la necesidad de anteponer la economía productiva y el bienestar social a la especulación y que este parlamento tal como proponía el grupo nacionalistas vascos

monetario internacional a que con sus actuaciones contribuya decididamente a la consecución de los propósitos marcados en los objetivos de desarrollo del milenio propugnados

de los principios democráticos y la justicia social por lo tanto se trata de transmitir la idea de que en el contexto de la unión europea debemos y podemos mejorar el funcionamiento de las instituciones

y de la política pero desde las mismas instituciones y no deshaciéndolas con discursos populistas demagogos y violentos como hemos escuchado al representante

puede ser la alternativa acabar con todo para implantar otro régimen todavía peor o peor mucho peor que el que tenemos que es lo que básicamente propone eh bildu

no puede en ningún caso afirmarse que las políticas europeas per se destruyen el estado del bienestar depende

y para eso están las votaciones y para eso está la democracia y para eso está el poder de la ciudadanía el pacto de estabilidad y crecimiento por ejemplo establece normas estrictas contra la deuda y el déficit público de los estados de la unión europea ahora bien no podemos olvidar que las recomendaciones de la comisión europea exigen recortar gastos y hacer reformas estructurales pero son los estados los que deciden cómo y dónde recortan y los gobiernos de esos estados los deciden con sus votos los ciudadanos

y educación es nuestro gobierno quien decide en qué partidas y sectores lo hace y dónde

no interviene y evidentemente puede criticarse el pacto de estabilidad y crecimiento y pueden criticarse sus propuestas y sus decisiones y pueden criticarse las actuaciones y nosotros las criticamos del fondo monetario internacional

que ciertamente tienen mucho que mejorar otra cosa evidentemente es acusarles de cometer crímenes contra la humanidad o de colaborar para cometerlos y se pueden y se deben cambiar

aplicadas y está en nuestras manos recientemente se votó en el parlamento europeo el presupuesto de la unión europea para el periodo dos mil catorce dos mil veinte

entre otros en la política agrícola común y los fondos estructurales y de cohesión entre ellos el fondo social europeo la iniciativa de empleo juvenil

etcétera etcétera etcétera es decir que desde la política desde europa desde las instituciones democráticas se pueden implementar los cambios que todos necesitamos

monetario internacional son instituciones que han faltado seriamente al objetivo que se les fue asignado es decir a mejorar el nivel de vida de los países miembro no se puede decir que el parlamente europeo sin embargo no haya sido suficientemente crítico

por la denominada troika ha sido crítico y nosotros también hemos sido críticos y por cierto en breve habrá unas elecciones al parlamento europeo para que se puedan conformar las mayorías o las minorías que el conjunto de los ciudadanos europeos en fin esa es por lo tanto la solución la política y en todo caso el futuro está en nuestras manos depende

y se trata evidentemente de impulsar medidas políticas desde la política desde la democracia para recuperar la decencia para recuperar la justicia social

para defender el estado del bienestar para luchar contra la desigualdad para luchar contra la pobreza y para defender el interés de la mayoría de los ciudadanos por lo tanto la solución a todos nuestros males es la democracia

no la antipolítica no la destrucción de todo que es lo que básicamente propone eh bildu en fin nosotros lógicamente votaremos por lo razonable votaremos por la democracia votaremos por el acuerdo alcanzado

una iniciativa como esta que pide lo que pide pues al principio no sabe si tomárselo a broma si es que

el paripé que sea pero después de oírle

y yo no sé usted como pensaba que vivían los habitantes de la tierra antes de la segunda guerra mundial si mejor o peor que hoy

todo eran democracias incluso la que usted plantea aunque no sea lo que los demás la planteemos

se vivía mejor antes de la creación del fondo monetario internacional y del banco mundial

ese es el planteamiento que usted nos está haciendo aquí yo le voy a explicar porque aunque sé que lo hace que lo sabe aunque sé que lo sabe

pero no sé por qué viene aquí a engañar o a mentir mire le voy a decir

ni sirve ni se crea para todo lo que usted ha dicho se crea para algo tan simple y tan sencillo

como para que el comercio internacional

para garantizar los pagos internacionales entre países para eso se crea que las deudas de unos países con otros se puedan pagar o para favorecer que se paguen para eso se crea para nada más

lo que es el fondo monetario internacional se crea para eso sabe cuántos países son miembros del fondo monetario internacional supongo que todos han pedido la entrada

apuntarse ciento ochenta y ocho países y usted viene aquí hoy a decirnos que hay que desaparecerlo

y ninguno de esos ciento ochenta y ocho países dice que se da de baja ninguno sino que cada vez que se crea uno le falta tiempo para apuntarse pero vienen ustedes

que hay que suprimirlo todos los países del mundo mundial están equivocados hasta algunos muy socialistas pero todos están equivocados según usted y por lo tanto hay que hacerlo desaparecer

para su información le diré que ahora sí tiene alguna función más

es en el sector financiero sabe qué países son los que hoy más dinero deben al fondo monetario internacional a ver si le suenan grecia e irlanda le suenan los del rescate de europa le suenan creo recordar que ustedes pedían que españa también

sí con todos con todos los demás grupos estos son los países que hoy deben más dinero al fondo monetario internacional porque desde hace muy pocas fechas sí tiene otros cometidos ahora le voy a explicar lo bien que se vivía en el mundo

y por qué y para qué se crea el banco mundial que textualmente decía con dos ambiciosos objetivos acabar con la pobreza extrema

la meta del banco es disminuir el porcentaje de las personas que viven con menos de uno coma veinticinco

al tres por ciento antes de fines del dos mil treinta esto es el primer motivo por el que nace el banco mundial

y el segundo para fomentar la prosperidad compartida la meta es promover el crecimiento de los ingresos de la población de todos los países que se sitúe

de la distribución del ingreso oiga fíjese lo bien que se vivía que fíjese con qué objetivos se crea el banco mundial

créditos sin intereses y donaciones a países en desarrollo

del mundo a usted no le gustará cómo funciona y a lo mejor a otros pues nos gustaría que funcionara mejor pero es que usted ha venido aquí a decir que se suprima perdón no solo eso usted ha venido a decir aquí

internacional la corte internacional por literalmente nos dice usted

al delito tipificado como de lesa humanidad en la corte penal internacional pero se le ha olvidado luego además es usted un poco incongruente porque usted nos dice que todos los males del mundo mundial provienen del banco mundial del fondo monetario internacional en colaboración con la unión europea y el banco central europeo y sin embargo usted no pide que se disuelva la unión europea y el banco central europeo ni tampoco pide que los juzgue el tribunal penal internacional oiga a los colaboradores necesarios del desastre del mundo

a qué ha venido usted aquí hoy pero en fin me he molestado

de la corte penal internacional son ocho artículos ocho artículos

como no podía ser de otra forma que está para juzgar personas y no organismos ni organizaciones

de los delitos de los crímenes de lesa humanidad le voy a leer textualmente lo que dice porque según lo he leído me ha empezado a sonar oiga pero no me tengo que ir ni a china ni a áfrica

a los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad

contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque asesinato

exterminio deportación o traslado forzoso de la población

torturas persecuciones de grupos o colectividades por motivos políticos etcétera y

cómo encaja cómo encaja lo que hemos vivido en este país algunos

y a lo mejor lo que estamos asistiendo aquí es a

y desvirtuar lo que significa el crimen de lesa humanidad claro como todo lo que ustedes tocan

a lo mejor hay más pero yo solo conozco uno en el que sistemáticamente el régimen

hoy y se llama corea del norte y lo sabe todo el mundo desde hace años y está matando a millónes de personas de hambre hoy

en ese tema sí sé que tiene que ver la unión europea que no hace nada ni la onu que no hace nada ni nadie que no hace nada

ahora a usted no le veo que a usted le preocupe mucho eso está pasando hoy

de hace veinte años treinta cuarenta cincuenta nos habla usted de dictadores oiga lo que está pasando hoy a usted le importa le interesa

tiene alguna idea para aportar algo para solucionar algo usted nos plantea

en el que participan más de ciento ochenta países del mundo en el que están voluntariamente nos dice que los quitemos para fundar otros dos

luego dicen no hay que democratizar estos organismos hombre democráticos son de hecho sus órganos de gobierno los eligen los socios los ciento ochenta países ahora esto

su dinero exige tener cierto control de su dinero

los estados unidos de norte américa pues sea el país que más dinero aporta a estos organismos

los americanos piensan que en fin con su dinero bromas las justas pero yo lo que le animo es a que ustedes desde la diputación de gipuzkoa aporten algo algo a algún organismo

que ustedes llevan tiempo ya sentados aquí y lo difícil que es moverlos cómo se nota

o con menuda compañía se han juntado ustedes señores y señoras del grupo socialista

que directamente nos ha hecho un discurso que podía ser asumido tranquilamente por cualquier partido neoconservador

todo aquello que se ha podido sacar desde el grupo euskal herria bildu a la palestra de verdades históricas que se han acometido

directo del fondo monetario internacional y del banco mundial ha negado la mayor y directamente dice que si se transforma que no es lo que más le gustaría pero si se pudiese llegar a transformar podría ser un órgano que cumpliese por lo menos con los derechos humanos o por lo menos

la generación de un mundo más solidario más justo económicamente pero es que euskal herria bildu negamos la mayor y la mayor es

que ya está podrido que está esclavizando a países enteros a toda la clase trabajadora está empobreciendo

estamos ustedes nos dicen que si se mejorase que si se democratizase o si fuese algo más transparente estaríamos mejorando sinceramente en las condiciones generales es imposible transformar esa institución es imposible con lo cual ustedes mienten y mienten también cuando nos plantean que directamente con la transacción que lo único que hace es

y llevarlo a unos aplausos y a unos ciertos tirones de orejas

ustedes nos quieren decir que es lo más lógico y lo más real

es la que está generando el empobrecimiento de millónes de personas en el mundo y como decía antes

es colaborador necesario y ustedes están haciendo ese papel

qué está pasando con la deuda y me ponían el ejemplo de grecia portugal e irlanda qué está pasando con grecia

está pasando algo que yo no haya traído a este debate no se está privatizando no se están eliminando las condiciones laborales y sociales

no se está vendiendo incluso o se les exige o se les plantea la venta directa de parte de lo que es el estado no se les está exigiendo nada de eso ese es su mundo mejor ese es un mundo mejor yo tengo claro que para el partido popular lo tiene clarísimo que sí sí

no vivimos una crisis no se está ajustando absolutamente nada ustedes están acaparando la riqueza

unos legalmente y otros ilegalmente como en su partido hablaba usted de que lo que habría que hacer ustedes comentaban es mayores políticas sociales que con más democracia se sale de esto

o simplemente con más democracia con su modelo democrático o representativo en el que las entidades financieras

cuáles son sus políticas cuando la población no está eligiendo absolutamente nada ustedes no participan de un sistema democrático libre participan del poder de las grandes empresas transnacionales y del poder del capital que nunca que los estados den por finiquitada su deuda ilegítima con las entidades financieras deuda que les ahoga y que por cierto es la que impide

que existe hambre y yo le voy a dar más ejemplos el estado español también

lleva años buscando en las basuras poderse llevar algo que comer lo están haciendo ustedes con sus recortes en política social eso lo está haciendo el partido popular y también lo está haciendo y fue corresponsable el partido socialista cuando modifica la constitución para poder pagar la deuda o ese es un mundo más social y mucho más justo ese es su modelo de justicia

de política social pagar la deuda sí a los bancos

les decía al principio quienes participan de esta estrategia son corresponsables el partido popular es corresponsable el partido nacionalista

de ese partido popular me gustaría preguntarles a ustedes grupo socialista

de qué lado van a estar con ellos o con los que proponemos que otro mundo es posible y que con estas estructuras no lo puede ser eskerrik asko

gracias presidenta buenos días de nuevo señorías hay un refrán español señor munain que dice

porque si usted trae aquí una iniciativa que dirá lo que diga y

intento empatizar con usted le planteo cuáles son las posiciones del grupo socialista con absoluto respeto

apelar a las compañías que uno pueda intentar aunar o no

aunque me parezca una burrada y se lo diré pero

no me parece que sea la mejormanera de hablar es decir no me gusta la estética de su discurso

pueda usted ni nadie especialmente venir aquí a destapar el tarro de las esencias con el tarro de las decencias porque no

en relación con esta proposición con lo que está pidiendo y no le hemos dicho le hemos dicho simplemente cuál es nuestro planteamiento y nuestro planteamiento es el que ha quedado clarísimo clarísimo yo creo que meridianamente claro y por eso ha suscitado el apoyo del resto de la cámara nuestra posición y la del grupo nacionalista que es mejorar las cosas usted lo que intenta es

que en fin que también tendría cosas que decir al respecto y mientras tanto

que lo que usted no plantea es decir lo que plantean los demás no tiene valor alguno no tiene valor alguno para usted parece que lo nuestro es un brindis al sol pero el problema es que el suyo también es un brindis un brindis al sol pero además usted se carga la vajilla

tenemos clarísimo cuál es la situación exactamente igual que ustedes

y eso es en definitiva el último fin de la política es intentar mejorar la vida de los ciudadanos y tenemos unas instituciones que no funcionan pero que de hecho por ejemplo economistas como alejandro nadal que no creo que sea sospechoso de nada da su valor

de las actuaciones del fondo monetario internacional no era mi intención

en ese periodo posteriormente las políticas neoliberales estamos de acuerdo nos han llevado a donde estamos

que lo que hace falta es una democratización del funcionamiento de esas instituciones unas instituciones que si cabe todos los estados miembros puedan tejer una serie de alianzas nuevas que permita establecer fundamentalmente

van a mejorar mucho las cosas de todas maneras si a usted le parece

descafeinada esta iniciativa esta enmienda transaccional

pero en cualquier caso como usted sabrá de pequeños pasos

lo he conseguido he conseguido ridiculizar la proposición no de ley de eh bildu

no sé si mi intención era esa simplemente he intentado constatar con mayor o menor fortuna

que me han ido surgiendo a medida que la he ido leyendo y la he ido analizando no quiero ridiculizar pero tampoco me gusta dar consejos esa es la verdad allá cada uno

y no es mala consejera la prudencia porque yo puedo entender los posicionamientos ideológicos incluso los posicionamientos ideológicos más extremos en la escala de colores pero cuando de tan extremos

resultan ser contraproducentes para uno mismo evidentemente antes creo que lo he dicho o por lo menos lo he intentado decir ninguno somos tan ciegos como el portavoz de eh bildu pretende

dejamos de ver las injusticias que existen y que se provocan en este mundo

y que efectivamente estos últimos años en europa principalmente y dentro del estado español y por estarlo básicamente

no tanto por las condiciones que ha puesto la troika

esa es la razón directa vamos a decir lo malo de las condiciones que ha establecido la troika con el fondo monetario internacional con el banco central europeo

porque el estado español ha requerido de prestamos

evidentemente quien da su dinero pretende que se le devuelva y en esa pretensión establece condiciones a cumplir no siempre

con lanzar balones fuera y buscar culpables lejanos de las situaciones que se producen

las culpas son mucho más cercanas yo no he pretendido ridiculizar pero el señor lópez de munain tampoco tiene mayores

al resto de los miembros de esta cámara o a nuestro grupo en particular

o con decirnos que somos estómagos agradecidos del sistema agradecidos de qué lo que estamos pretendiendo es aplicar políticas sociales humanistas sí efectivamente humanistas estamos

el progreso social y económico y establecer principios sostenibles de justicia social porque

tienen necesariamente que ser sostenibles porque si no lo son en balde en balde haremos

posicionamientos extremos como los que el señor lópez de munain nos ha planteado y desde luego hay una cosa que efectivamente a mi no gusta y es

y hay frases enteras que le he escuchado decir aquí que me han parecido el ejemplo más nítido de lo que es

se me ha olvidado recordarle antes por si no lo sabía usted que en la segundo guerra mundial

son los que lucharon contra esos fascismos y nazismos y ganaron la guerra

y gracias a eso digo por recordarlo porque es que parece que ganaron los otros

recordarlo y que no nos equivoquemos de qué estamos hablando ni quienes eran unos

a mi me preocupa una frase suya se la voy a intentar explicar muy breve porque sé que es inútil

cuando usted habla de que solo se puede ayudar a países que cumplen los derecho humanos

su planteamiento pues este es un debate

cuando menos importante porque claro los países más empobrecidos precisamente no es donde se cumplen los derechos humanos

y cuando usted hablaba de la deuda eterna sobre todo de sudamérica el problema cuál era que el banco mundial prestaba dinero o que otros países

luego que ocurría con él y luego había que devolverlo claro había devolverlo

según usted qué había que haber hecho no dar ningún crédito hasta que sean democracias bueno hay otros que pensamos que en fin pues que es mejor

usted me dice que nuestro modelo es pagar la deuda y sí es que cuando necesitamos pedir prestamos porque no nos llega el dinero pues todo el mundo sabe salvo usted que primero tengo que pagar los prestamos que debo porque es que sino

salvo usted con perdón que usted no lo sabe no debe estar en esa situación yo si debo yo si tengo prestamos yo sí debo dinero o sea yo sé

posteriormente primero voy a tener que pagar el primero porque si no pago el primero nadie me va a prestar dinero luego a usted sí a mí no

a mí no qué quiere que le diga yo sé que a mí no me lo van a prestar a usted ya sé que sí a ustedes sí debe ser que tienen un aval y un crédito mayor que los demás yo sé que a mí no me lo van a prestar

y los países es igual y evidentemente si hoy

esta comunidad autónoma le voy a recordar que vamos a pagar de intereses este año y de amortización de deuda cuatrocientos millónes de euros y el año que viene ochocientos

a lo mejor resulta bueno perdón bildu igual nos los presta porque ustedes no tienen problema y además serían capaces de prestarnos el dinero a todos

sin interés porque su modelo es no pagar los prestamos con lo cual

y al señor gatzagaetxebarria habría que decirles que se pongan en contacto con ustedes que van a conseguirnos una financiación gratis todos los años de más de mil trescientos millónes de euros porque ese es su planteamiento

tenemos otros problemas por eso nuestro modelo sí es pagar las deudas

pues es nuestro modelo sí pagar eso que a usted se le llena la boca hablando de hay que salvar el estado de bienestar sí pues cuesta dinero y hay que pagarlo y a los funcionarios y hay que pagarles y si hay que pedir prestamos pues se piden los prestamos pero claro luego hay que devolverlos y sí ese es nuestro modelo el suyo ya sé ese modelo pero le voy a decir una cosa con su modelo y sus democracias yo solo sé que cuando su supermodelo durante muchos años que era la urss que era un modelo tan bueno de unas libertades tan fantásticas que se tenían que levantar muros

no se fuera de esos paraísos terrenales de lo bien que se vivía de lo bien que se vivía según se fue aflojando y la gente pudo decidir algo no parece que ese modelo socialista suyo
haya triunfado en todos esos países sino todo lo contrario eskerrik asko damborenea jauna

proposición no de ley que presenta el grupo socialista hoy es para impulsar

o tratar de que se garantice la ejecución de las obras previstas porque

es una marca de éxito y es el éxito de un trabajo conjunto entre distintas instituciones gracias a bilbao

la ciudad de bilbao ha tenido una regeneración urbanística espectacular ha actuado además como motor económico

desde el inicio la inversión total han sido novecientos ochenta y cinco millónes de euros ha funcionado con una colaboración

ejemplar entre las instituciones el cincuenta por ciento

del estado y otro cincuenta de ámbito autonómico ha funcionado con generosidad y altura de miras

ha habido generosidad también en la aportación de bienes o de fondos para llevar adelante la actividad puesto que

con suelos provenientes del estado

no voy a dejar pasar el orgullo que me produce el que se inició el impulso

posteriormente en todo el desarrollo y ejecución de los trabajos de bilbao ría dos mil sin embargo este año es verdad que se ha puesto en cuestión la continuidad de bilbao ría dos mil y hay razones para analizar qué pasa ahora mismo

financiera pero lo que es indudable es que hay obras pendientes por acometer o por terminar en bilbao por ejemplo

que está previsto que se acabe para el dos mil dieciséis finales del dos mil dieciséis está pendiente

en barakaldo está prevista y creemos que se ejecutará la urbanización de la calle el carmen y la pasarela por encima de la estación

es decir no solo una pasarela es la integración de distintas partes de la ciudad parte de ella proveniente de una regeneración urbanística

es algo a lo que no podemos renunciar también previsto para eso

quizá dos mil diecisiete hay otras obras pendientes en barakaldo como es la urbanización junto a la avenida de altos hornos y otras zonas

en basauri también han quedado actuaciones pendientes

proposición no de ley que hoy presentamos de la culminación de los proyectos pendientes hasta dos mil diecisiete sin que eso prejuzgue la evolución de la sociedad la realización de nuevas actuaciones pero vamos a garantizar en la discusión en el contexto de la discusión que se ha producido este año la

de esas obras además vamos a abordar la situación de la empresa que ahora mismo no es buena

es de ciento setenta y siete millónes de euros ahora mismo y tiene

parcelas por vender estimada la venta en doscientos diecinueve millónes

que tiene un pequeño desfase que habría que actualizar en la coyuntura actual del mercado tendría alguna baja pero aun así con esos números estamos hablando en total en balance entre la deuda de los bancos y las parcelas por vender de cincuenta y seis millónes de salgo positivo en el balance total si todo se ejecutara en esos términos que probablemente

pero hay que analizar qué se puede hacer porque posibilidades hay la propia sociedad ha analizado es público distintas posibilidades análisis que está aún sin culminar sin precisar del todo uno de ellos es la

pero permite la continuidad hasta que se haga un plan estratégico de viabilidad una decisión para el futuro sobre la sociedad

que pueden aportarlo de forma dineraria o con nuevos suelos otra alternativa que

ni en el futuro en el contexto en que nos estamos moviendo de una forma

la liquidación que si la cito es porque

alguno este año lo ha dicho expresamente la liquidación digo que no parece una solución viable porque aunque pretendan con eso quitarse el problema de encima resulta que

deberían de aportar para liquidar la deuda

supondría al conjunto de las instituciones que representan al estado en la sociedad ochenta y uno millónes de euros aproximadamente y otro tanto a las autonómicas

tendría que aportar de eso veinticuatro millónes y medio más doce millónes y medio que le quedan por pagar de la operación

serían treinta y siete millónes de euros en unas cuentas

porque en la transacción alcanzada entre el partido popular y el pnv se habla

que no se perjudique los servicios o algo así imprescindibles de las administraciones públicas pues bueno pues estamos hablando que solo en el ayuntamiento de bilbao treinta y siete millónes si liquidamos

aunque estos son números aunque hay trabajos pendientes aunque hay muchas razones para pararnos y pensar cómo hacer posible

hay otro valor enorme de esta sociedad es un foro que reúne a los propietarios y a los operadores de las líneas ferroviarias

a los responsables de transporte y vivienda del gobierno vasco y de la diputación foral de bizkaia todo esto es algo impagable si no existiera tendríamos que reinventarlo

conurbación que tiene que estar integrada que va desde galdakao

en esa conurbación la única posibilidad de integrar un funcionamiento ágil

eficaz y eso integrado es tener una visión estratégica de todos los agentes que pueden posibilitar esa actuación

a la vez aportando todos y tratando

también desde ahí los proyectos que con ese fin se planteen por lo tanto lo que significa bilbao ría dos mil es necesario motor económico

integración territorial es necesario ahora bien hay que ver cuáles pueden ser las soluciones por eso no cerramos puertas

hablamos de que se haga un plan de viabilidad porque solo se está hablando de medidas urgentes muy concretas que todavía no se conocen y que no solucionan ni lo que unos quieren solucionar que es el asunto financiero ni solucionan que la necesidad

sea también una realidad en el futuro hay otro aspecto en lo que se está hablando que tampoco

se quiere decir en público muchas veces por algún partido y es la situación de los trabajadores de la empresa que no son más que veintidós

lo que es un éxito ha sido y deberá de seguir siendo una actividad importante

si en este tránsito por mor de que la actividad

reestructurar que probablemente haya que reestructurar de alguna forma

eso como se acordó en un consejo de administración hace ya meses debería de hacerse atendiendo a las circunstancias personales de cada uno buscando jubilaciones

hacer con un tratamiento por supuesto digno en las indemnizaciones y meses después nos encontramos con que esta semana ha habido otro consejo de administración

en el tratamiento del personal y eso también yo creo que desde aquí debemos de cuidarlo no podemos solo hablar

de los que han hecho posible la empresa que no se trata de buscar nada especial sino de un tratamiento

y además racional bien pensado hablado con cada uno en la reestructuración que se estime necesaria para acabar recordar que este modelo de bilbao ría dos mil es un modelo francés

se copió el modelo francés de colaboración público

para financiar actividades de suelo público colaboración entre las instituciones también depende de cuál de las sociedades intervenga y hoy en francia ha habido

gracias a doscientos cincuenta y dos sociedades de este tipo que están funcionando en francia y a pesar de la crisis que se atraviesa en vez de ir para atrás este año han creado

una perspectiva de alguna altura de pensar que la integración urbanística el futuro de las ciudades pasa por actuaciones

del tipo de bilbao ría dos mil por eso instamos para acabar

que garanticen la culminación de los proyectos pendientes

arbitrados y otros que deberían arbitrarse porque son

que han pillado el desarrollo urbanístico cuando han venido las vacas flacas mientras que bilbao ha tenido la suerte de tener un desarrollo esplendido

la solidaridad territorial exige que al menos el mínimo de actuaciones previstas se lleve a efecto no establezcamos una diferencia mayor entre la capital y el resto de ciudades del territorio cuando es responsabilidad de todos y los terrenos de barakaldo se han aportado también para la regeneración de bilbao

un plan de viabilidad razonable de futuro que no se ha hecho yo creo que hay que buscar

por eso lamento que no haya sido posible un acuerdo entre los distintos grupos que han enmendado

pero hay por una parte en el punto dos de la transacción se refiere únicamente a decisiones que mejor garanticen el interés público pero el interés público es todo en una actuación de este tipo hay que apuntar

qué cosas al menos se deben abordar en el futuro aunque no sea de forma cerrada y en el punto tres que es más difícil aún de compartir se habla

hay que evitar endeudamientos incontrolados o actuaciones gravosas que hipotequen las inversiones o servicios esenciales que deben realizar las administraciones públicas me parece

que se cargue sobre bilbao ría dos mil el problema que pueda tener

cualquier administración pública que colabore porque entre otras cosas bilbao ría dos mil

independiente de los presupuestos de cualquier administración y hay muchas sociedades públicas con muchas pérdidas y no voy a citar ahora mismo en fin a ninguna con más pérdidas que bilbao ría dos mil y siguen funcionando al amparo de la ubre pública por lo tanto

acuerdo y aún así espero cosa que no es frecuente

en esta época parlamentaria haberles convencido gracias eskerri asko

muchas gracias señora presidenta señor vicente reyes yo creo que todos o casi todos los que estamos aquí sabe que compartimos que bilbao ría dos mil ha sido un éxito y eso es lo que refleja nuestro primer punto

de la enmienda que hicimos y el que va en la enmienda de transacción ahora también hay que recordar

también hay que recordar las cosas es un éxito de colaboraciones interinstitucional

el gobierno de españa con los terrenos que tiene ahí el que financia absolutamente todo que algunos lo llamarán especulación otros recalificación pero bueno a base de recalificar esos terrenos y venderlos aquí

compra esos terrenos esos solares paga ese dinero y con ese dinero

mientras funcione relativamente bien y funciona tan relativamente bien e incluso

que se van ampliando cada vez más proyectos a bilbao ría dos mil algunos que no estaban evidentemente ni planteados ni planificados en su momento y ocurre

con muchas cosas pues que ese sistema de financiación pues ya no financia y cuando ese sistema de financiación ya no financia

que falta dinero hay que emitir deuda y luego hay que pagarla porque hay que pagarla y también bilbao ría dos mil tendrá que pagar la deuda que tiene no es lo mismo

que durante muchos años se han hecho unas inversiones y unas obras muy importantes y un desarrollo económico muy importante sobre todo en bilbao

pero a costa de no tener deuda ninguna de las administraciones que estaba ahí como usted mismo dice hoy

de deuda no contabilizada no contabilizada como tal y luego les da algunos alcaldes para decir yo no tengo deuda

contabilizarla pero es evidente que se debe y es evidente que habrá que pagarla y que a todos nos gustaría

pudiera seguir con barakaldo con basauri

con galdakao y que la fórmula de financiación fuera la misma que inicialmente existía

cuando el problema ya es que para hacer esas obras que no digo que es el caso de ahora pero otras a futuro porque

propuesta de mayo hablaba ya claramente del cierre de la sociedad y el problema no eran las infraestructuras sino el personal de la sociedad

pues supongo que tendrá los mismos derechos que les corresponden como a todos los demás trabajadores de una empresa o de una sociedad como esta no entiendo la preocupación

del señor reyes con este tema pero sí es evidente que ya no es lo mismo

una sociedad se financie con el producto de la venta de terrenos o de solares a que haya socios en esa sociedad que tengan que endeudarse para pagar obras en las que a lo mejor ni pinchan ni cortan ni son competentes por aclararnos un poco en algunas materias sobre todo cuando estamos hablando de obras municipales muy concretas y por lo tanto nosotros en esta materia estamos

no tenemos ningún empacho en reconocer que evidentemente fue en época de un presidente socialista cuando se constituye bilbao ría dos mil

no es menos real que es durante un presidente del partido popular donde se desarrolla todo y se hace casi todo y

digamos el superávit se convierte en deuda y que evidentemente todas las administraciones que están ahí sentadas dicen ojito

con el que participa en la sociedad y por lo tanto nosotros en esta materia sí le damos un margen de confianza al consejo de bilbao ría dos mil no tenemos ninguna duda que van a hacer

lo mejor para todas las administraciones públicas que participan ahí y lo que no entiendo es por qué al señor reyes no le gusta el tercer párrafo de nuestra proposición

las sociedades públicas deben regirse por los principios de rigor eficiencia económica viabilidad de sus funciones y un objetivo público

endeudamientos incontrolados yo supongo que usted está de acuerdo con todo esto digo décimos para evitar endeudamientos incontrolados

esenciales que deben realizar las administraciones públicas yo le voy a poner el mismo ejemplo que usted ha puesto si el ayuntamiento de bilbao no tuviera treinta millónes de euros de deuda hoy podría disponer de treinta millónes de euros para otras cosas

pero si al final lo que tiene que hacer es pagar treinta millónes de euros de deuda aquí pues es evidente

y le hablo del ayuntamiento de bilbao le hablo de la diputación le hablo del gobierno vasco le hablo del gobierno de españa le hablo del ayuntamiento le hablo de todas las instituciones y a nosotros sí nos parece que es correcto y razonable que los responsables de gestionar una sociedad

su primer objetivo tiene que ser el interés público

gracias presidenta creo que como ya se ha dicho hay cuestiones que todos o casi todos compartimos en esta cuestión

por bilbao ría dos mil durante los últimos años se creó

los éxitos logrados por la sociedad en la regeneración urbanística de bilbao la colaboración indispensable de los diferentes gobiernos de españa

y un ejemplo de colaboración interinstitucional creo que ejemplo de un trabajo bien hecho que como consecuencia de sus actuaciones

de euskadi que sin este instrumento el desarrollo de algunos proyectos seguramente habrían sido

mantener una visión estratégica del desarrollo al margen de las luchas partidistas o partidarias y que ha sido un éxito y que su labor ha sido incluso reconocida internacionalmente consiguiendo premios de prestigio creo que esto

compartimos el éxito por lo tanto pasado de esta

por todo esto me parece razonable me parecía razonable y me sigue pareciendo razonable que tal y como proponía el partido popular agradezcamos y felicitemos a bilbao ría dos mil tanto a la dirección como a los trabajadores el trabajo realizado en nuestra opinión el papel de la sociedad podría seguir estando teóricamente vigente sería deseable que pudiera

el trabajo que ha realizado hasta ahora el problema es si efectivamente puede desarrollar ese trabajo que algún grupo le pide teniendo en cuenta cuál es la situación

y por eso ciertamente también me parecían razonables y me siguen pareciendo razonables las enmiendas planteadas por el grupo popular y por el grupo nacionalistas vascos y también la transaccional que han alcanzado creo que es el propio consejo de administración de bilbao ría dos mil el que tiene que plantear alternativas

seguir llevando a cabo las infraestructuras o las obras urbanísticas planeadas hasta dos mil diecisiete y si puede hacerlo adelante pero creo que tampoco se trata de mantener la sociedad de forma artificial o provocando

infinito e insostenible en una especie de huida

sin bases sólidas cuyas consecuencias pueden ser peores y efectivamente lo que han propuesto algunos ha sido el cierre ordenado de la sociedad pública como mejor opción o como opción menos mala es decir la liquidación lo último que sabemos o lo que sabemos a día de hoy la difícil situación financiera en la que se encuentra el crack financiero que algunos han señalado en los últimos tiempos

la disminución del valor de sus activos y creo que ante esta situación pues es posible que lo mejor o lo menos malo sea la liquidación pero en todo caso tampoco descartamos que sea el propio consejo el que evalúe la situación y tome las decisiones

en fin en todo caso y vistos los argumentos que se han expuesto en el debate de ahora vistos los argumentos también visto el debate que ha habido recientemente en las juntas generales de bizkaia la situación de la sociedad

de que teníamos una enmienda de totalidad me parece que es razonable lo que se propone

que se felicite a bilbao ría dos mil por los éxitos conseguidos me parece razonable decir que sus órganos sociales adopten las decisiones que mejor garanticen el interés público y también me parece razonable recordar que las sociedades públicas deben regirse por los principios de rigor y eficiencia económica

de la transaccional ya digo me parece razonable más allá de respetar por supuesto la iniciativa original y por eso finalmente vamos a votar a favor de lo que han firmado grupo nacionalistas vascos y grupo popular gracias

bai eskerrik asko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on guztioi estamos ante un tema que ya ha sido tratado en otras instituciones en concreto en el ayuntamiento de bilbao el pasado veintisiete de junio a instancias de bildu

el pasado diecisiete de octubre en una proposición no de norma del partido socialista y en ambos casos los propósitos y argumentos de unos y otros eran antagónicos

reclamando transparencia y la celebración de un consejo de administración de tipo asambleario

y la realización de las actuaciones pendientes hasta el dos mil diecisiete como aquí también hemos visto ninguna de estas dos iniciativas salió adelante en esos dos foros

en la única institución que actualmente gobierna el partido y proponente de las que forman el

me estoy refiriendo al ayuntamiento de barakaldo que es propietario del cinco por ciento de la sociedad

presentó en sede parlamentaria el pasado veintisiete de marzo una proposición no de ley a este respecto quizás como recordaba el señor damborenea adelantándose en exceso a los acontecimientos ya que la misma bueno los tres párrafos empezaban bilbao ría dos mil prepara su disolución

la sociedad está adoptada y a continuación se solicitaban una serie de medidas que estaban poniendo la venda antes de tener la herida si bien

con fecha trece de septiembre de un tenor literal exactamente igual que la presentada por el grupo socialista en las juntas generales de bizkaia

incorrección o se hace alguna afirmación que no se corresponde totalmente con la realidad en primer lugar indicar que a fecha de hoy y ayer se celebró un consejo de administración de la sociedad

a fecha de hoy lo que existe es un acuerdo tomado por su consejo de administración encargando que se analicen distintos aspectos relativos a la sociedad para que sus órganos sociales adopten las decisiones que se estimen oportunas en lo relativo al cierre ordenado o a la continuidad de la sociedad

anunciase ante el consejo la posible liquidación de la sociedad esto no coincide con los hechos y además en ningún caso podía haber correspondido al director general anunciar algo de tal entidad que quedaría

realizadas estas matizaciones para nuestro grupo euzko abertzaleak es evidente pero no por ello vamos a dejar de significarlo en esta cámara y así se refleja en la transaccional con el grupo popular el valor fundamental que ha tenido esta sociedad pública

para resolver temas urbanísticos donde concurrían competencias de distintas administraciones dejando

permitiendo a los ciudadanos incrementar su calidad de vida y recuperar el gusto por la ría recuperando unos espacios que antes

con miles de puestos de trabajo perdidos por la desaparición de la industria pesada además la mayor parte de las actividades portuarias

sus muelles de ribera y renfe trasladó sus instalaciones también lo que supuso

ofreciendo una oportunidad histórica de regenerar la ciudad incorporando la ría a la urbe y ahí están los resultados

para poder proceder a los cambios que en momento de su creación se entendían estratégicos

el cambio de modelo de ciudad que se deseaba y poder así llevar a cabo una birgestión del planeamiento

se debe a un ejemplo que quizás debiéramos seguir más al que han sido capaces de llegar a acuerdos las diferentes administraciones y estando gobernadas por distintos partidos políticos

en obras publicas parques paseos carreteras infraestructuras ferroviarias instalaciones deportivas etcétera sin recurrir como aquí se ha puesta de manifiesto hasta la fecha a los presupuestos públicos ya que los ingresos

para la construcción de viviendas oficinas y otros equipamientos y con la correspondiente entrega de obras infraestructuras públicas a sus socios algunos ejemplos de las principales actuaciones son la variante sur ferroviaria abandoibarra amezola bakaraldo con urban galindo operación garellano etcétera

el problema actual que también aquí se ha puesto de manifiesto es que la crisis ha hundido el valor de esos suelos además

por lo tanto como se ha dicho anteriormente no está absolutamente decidida la disolución de la sociedad bilbao ría dos mil

que a treinta y uno de diciembre de este año se situará en unos ciento cincuenta y cinco millónes de euros continuando eso sí con el proceso de reducción de dicha deuda mediante la desinversión de los activos de que se disponen aún y que están valorados en el dos mil diez con un valor de doscientos ochenta y uno millónes de euros

está soportada mancomunadamente por sus accionistas y por los activos de la sociedad cuyo valor se ha ido deteriorando de manera considerable fruto de la crisis

puesto que hasta hace unos meses los representantes socialistas han formado parte importante del consejo de administración

la realización de un informe en el que se contemplaran diversos escenarios de cara a tomar decisiones sobre el futuro de la sociedad y a día de hoy se está a la espera y nuestra postura en este sentido

se estudie por las instituciones participantes y que se adopten las decisiones que mejor garanticen el interés público el interés público señor reyes que no es algo etéreo

hablaremos de ello y también se lo ha dicho el señor damborenea podemos hablar del dos mil diecisiete como ustedes indicaban en su propuesta pues a fecha de hoy no lo sabemos puede ser dos mil quince puede ser dos mil dieciséis o puede ser dos mil veinte hay que esperar a ese informe y conocer lo que opinan los socios

como consecuencia de la problemática del valor de los suelos se han ido tomando decisiones necesarias y así se adoptó el acuerdo de finalizar las obras que estaban en ejecución pero no comenzar

y las actuaciones en marcha que constituyen los únicos encargos de que dispone la sociedad en la actualidad son

además del proceso de comercialización de los numerosos e importantes solares con los que cuenta la sociedad

por otro lado la cuestión fundamental y por la que no hemos conseguido llegar a un acuerdo con el grupo socialista de su propuesta es la indicación de la garantía de la realización

que están pendientes nosotros siguiendo el criterio adoptado por el consejo de administración defendamos

se garantizase la finalización de las obras que están en curso esas que el señor reyes hablaba que finalizarán probablemente para el dos mil dieciséis pero no el comienzo de ninguna otra obra nueva que como idea está muy bien el que se garantice

se ha hecho mucho pero quedan muchas cosas por hacer pero hace falta más que la idea hace falta facilitar soluciones la clave es plantear cómo se van a financiar esas obras

vayan a poner dinero de sus presupuestos para realizar actuaciones en basauri pues creo que no es tener los pies en el suelo en este momento esto que queda muy bien

decir saca otra ronda que ya la pagará alguien creo que debemos hacer un ejercicio de responsabilidad y prudencia

y ahí es donde decía el tema del interés público eso es lo que entendemos nosotros por interés público y lo hemos concretado bastante más que el señor reyes creo que quede claro

a que se acometan y finalicen las denominadas actuaciones pendientes más bien al contrario se está trabajando por ello pero habrá que estudiar cómo

el horizonte de vida de bilbao ría dos mil está cubierto hasta finales del año dos mil catorce siendo el dos mil quince cuando se alcanzaría de lleno la situación de crisis financiera con la amortización de cien millónes de euros de la deuda

tras los escenarios que se planteen en el informe mencionado con todo rigor y eficiencia económica

y se tomaron algunas decisiones es evidente que con la situación actual la sociedad no puede soportar nueve millónes de euros de intereses al año

y se reconoce la labor que se ha hecho como también se manifiesta en el punto primero

y ante una situación de quebranto de caja pues la misma pregunta señor reyes quién va a pagar quién paga

la legalidad vigente y los posibles agravios comparativos con el personal de otras sociedades públicas y también teniendo en cuenta ese

es evidente que es necesario una readecuación de la plantilla por la lógica bajada de trabajo de la sociedad si tiene menos volumen de trabajo pues lógicamente las veintidós personas están infrautilizadas

racionalización de la administración pública y estamos ante un caso evidente

y el anunciado apoyo del señor maneiro besterik ez eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

la falta de información es una de las cuestiones que nos preocupan isiltasuna mesedez

porque creemos que una sociedad pública que gestiona suelo público y formada solo por administraciones públicas debería haber transparencia gaur

diren administrazio guztiek es decir todas las administraciones públicas socias de bilbao ría dos mil comprometieron sus recursos económicos y sus presupuestos

agujero financiero que pudiera aparecer y en esas estamos eta orain zer

bueno es muy curioso que tenga que repetir lo que dice la proposición no de ley por que cuando no se tienen argumentos señor zorrilla y uno sobrevuela

pues entonces tiene que llegar a desvirtuar lo que dice la proposición no de ley la

no habla de que se tenga que mantener y esto es para todos los que han intervenido a cualquier costa no no ni que haya que despilfarrar dinero público

un plan de viabilidad que eso yo mismo he dicho tendrá que ir con una reestructuración de personal pues claro que sí solo que con condiciones dignas para el personal

que la indemnización sea razonable porque el pnv se opuso aquí a la aplicación de la reforma laboral y por lo que estoy entendiendo

el pp ya sé pero el pnv con veinte días por año lo que estoy entendiendo

entre lo que se dice y lo que se hace se habla también de proyectos que deben de finalizar claro que sí pero fíjese y luego que se analice lo que se puede hacer es más me interesa más

no se puede perder lo que significa en riqueza de regeneración urbanística y de integración

no se puede perder la idea de bilbao ría dos mil se puede reinventar pero no es un error cerrarla sin alternativa bien dicho usted señor zorrilla que no es realista que

y además concreta más diciendo que el único pendiente es lo que está por hacer lo ha citado expresamente está grabado en bilbao bueno en bilbao

hay actuaciones en marcha están presupuestadas están comprometidas

no solo las otras es que es lo que ha dicho y fíjese lo que subyace en lo que dice una insolidaridad

en lo que supone la cohesión territorial cuando los terrenos que están en barakaldo que son del estado sirvieron para pagar obras en bilbao

cuando alguien ha hecho una regeneración urbanística espléndida barakaldo o basauri no pueden hacerla eso indica mucho también de cuál es la visión

una macrocefalia bien atada y el resto

eso lo indica muy bien quebranto de caja quién paga oiga

de que tiene que pagar sí o sí las instituciones que

y la alternativa es yo he citado tres escenarios posibles

pero sí o sí hay que dar una solución que pasa por aportar y eso no es una concepción

señor damborenea es atender efectivamente a las responsabilidades adquiridas

de reestructurar de buscar un plan de viabilidad pero lo que no se puede hacer es parece

pero nos vamos a librar no no no van a tener todas las administraciones públicas que acudir y hay algo que no entiendo dónde está el interés público

ni mantenerlo a cualquier costa estoy diciendo acabar proyectos hacer algo ordenado y un plan de viabilidad pero díganme dónde está el interés público cuando

responsabilidad exclusiva construcción funcionamiento gestión del partido nacionalista vasco cuando tiene números rojos todos los años gastos de déficit de explotación treinta y uno coma siete millónes que lo pagamos todos dónde está la sensatez oiga liquide el bec yo no quiero eh yo quiero

a ver si son capaces de hacerlo de una vez pero oiga liquide dónde está

no verdad claro porque las decisiones no se toman solo por los números hay que tomarlas con los números hay que evitar el despilfarro público

el interés social la viabilidad de los proyectos y lo que supone no haríamos nada interesante en el país si no pensáramos también en términos de lo que supone un proyecto y bilbao ría dos mil la marca bilbao ría dos mil sobre todo el funcionamiento lo que significa bilbao ría dos mil eso independientemente de todo deberíamos de salvarlo para tener un buen futuro

muchas gracias señora presidenta señor reyes yo

no sé si le entiendo bien creo que

que a los trabajadores de esta sociedad pública tengan que tener en fin privilegios mayores que otros trabajadores de otras empresas públicas o del sector privado

con justicia y hasta la fecha que yo sepa no se ha planteado nada con ninguno ni siquiera un ere y a lo mejor era una de las cosas que hace meses que se tenía que haber planteado en ese consejo de administración pero es que a día de hoy

y hay que pagarla porque es lo razonable sí y yo antes también he dicho que las deudas hay que pagarlas que es lo razonable

pedir más créditos para funcionar que es digamos la situación en la que está hoy bilbao ría dos mil porque como la única financiación posible viene del crédito de pedir más créditos

nos parece que ya llegando a una deuda que ha estado rozando los doscientos millónes de euros nosotros no estamos dispuestos no nos parece bien no nos parece correcto desde luego ese no es el interés público tener una ruina como la que tenemos en el bec y no hace tantos meses yo aquí ya propuse además si hace falta vender pabellones del bec para financiar algo que se vendan por que para estar vacíos y recogiendo polvo

mejor si los vendemos mejor si sacamos algo y mejor si nos ahorramos parte de la deuda que al final tendremos que pagar entre todos y por eso

nosotros planteábamos que efectivamente que las sociedades públicas

para lo que tienen que estar pero no pueden convertirse en un bec porque si cada una de ella se convierte

o el de barakaldo todas tendrán que dedicar su dinero a pagar las deudas de estas sociedades y nosotros repito para nosotros bilbao ría dos mil ha sido un éxito bilbao ría dos mil se podía haber cerrado hace muchos años cuando cumplió sus objetivos iniciales pero como funcionaba bien y había financiación

las posibilidades de hacer cosas lo cual estaba muy bien y todos estábamos de acuerdo

que reconocer que era un chollo para las administraciones que participaban

y mientras no se encuentre una solución a quién pone el dinero nosotros desde luego lo que no estamos por la labor es de seguir incrementando la deuda que tiene hoy bilbao ría dos mil y por eso nosotros estamos de acuerdo

tome las medidas mejores para todos los socios de ese consejo de administración que son administraciones públicas y es obligación de todos ellos velar por el interés de todos los ciudadanos

eskerrik asko presidente andrea mire señor reyes tengo poca experiencia en sede parlamentaria

me ha servido para ir conociendo algunas personas de esta cámara y

el de cuando no tiene argumentos acusar de manera clara de mentiras de descalificaciones no es mi estilo y no suelo mentir suelo decir la verdad y bastante clara y bastante clara

es que usted a veces no escucha decía que en su proyecto no de ley

bueno pues yo creo que no es así yo creo que no es así no voy a decir que miente pero

y no es porque lo diga yo tengo la proposición no de ley que presentó el veintisiete de marzo

con la que ha presentado en septiembre dice primer punto acordar y poner en marcha alternativas que garanticen la ejecución de las actuaciones en curso y que se hagan las que estaban previstas
y le recuerdo que si no hemos llegado a un acuerdo con usted isiltasuna mesedez ha sido

y usted insistía en que las que estaban pendientes o sea no estamos hablando de lo mismo

respecto a la visión del pnv respecto de bizkaia pues bueno yo creo que los ciudadanos y ciudadanas de bizkaia

cuál es esa visión y no le quiero recordar lo que me decía esta mañana respecto a la proposición no de ley de que bueno que no nos comprometemos a nada y que dentro de poco hay elecciones pues nosotros somos más serios y más responsables que todo eso no pensamos en las elecciones

en el interés público en una cosa le voy a dar la razón de lo que ha dicho lo último en que hay que mirar los números la viabilidad de los proyectos

el interés público respecto a la señora pinedo

creo que ha quedado claro en las intervenciones anteriores que la sociedad no se ha liquidado me ha parecido entenderle que se había liquidado la sociedad perdón

al que he hecho referencia en el que se encarga que se analicen distintos aspectos relativos a la sociedad para que los órganos sociales

o a la continuidad de la sociedad bueno el discurso de bildu tampoco nos ha sorprendido piden más transparencia y participación

tienen seis instituciones a través de las cuales pueden recabar información sobre bilbao ría dos mil el ayuntamiento de basauri el de barakaldo el de bilbao las juntas generales

donde además tienen representación en todas y pueden solicitar cuanta información deseen

están los que tienen que estar y no creemos que dicho consejo tenga que convertirse

a nosotros nos gustaría saber en cuántos consejos de administración de las instituciones que gobiernan ustedes se constituyen en asamblea dicen que especulación que no compartimos esa apreciación nosotros no entendemos la especulación como ustedes están diciendo todos los beneficios que se han obtenido mediante las plusvalías generadas

al servicio de la sociedad han sido mil quince millónes de euros que ahí están que se han dedicado

y que no han ido a la basura y a este respecto me viene a la memoria algún otro tipo de gestión que sí consideramos ruinoso

lo que tenemos muy claro y los ciudadanos y ciudadanas también es lo que teníamos y lo que tenemos a día de hoy lo que ha supuesto la transformación y regeneración de bilbao y su entorno metropolitano

de turismo brevemente le voy a mencionar hay un informe de la upv de marzo del dos mil doce

las actuaciones de bilbao ría dos mil del dos mil seis al dos mil diez y con una inversión media de setenta y seis millónes de euros al año

del orden de ciento cinco millónes de euros en los cinco años dice que es un modelo que nunca han compartido

me sorprende porque creo recordar que alguna persona que ha sido propuesta por ustedes para formar parte del consejo de administración de e i te be ha estado unos cuantos años en el consejo de administración de bilbao ría dos mil y algún otro concejal como el señor barainka de bilbao parece

y para otros de ustedes no les supone nada porque han estado ausentes y en silencio por qué pues quizás simplemente porque no tienen

como casi siempre están ustedes en las antípodas y de lo que piensan los ciudadanos

y la utilidad para los ciudadanos de esta sociedad y como estamos terminando el pleno mencionar una situación que me parece que en alguna ocasión tienen que sentir desde eh bildu que es que del de aquel que va en el coche que va por la autopista y oye por la radio atención

y dice uno si van todos yo creo que en algunas ocasiones

podemos solicitar información y recabar información en diferentes instituciones en las que tenemos representación ayuntamientos y demás no

su compañero el señor areso contestaba a preguntas

que había cosas que creía que no le podía decir en un pleno que no le podía contestar

cuando sus propios compañeros están negándonos esa información en la institución en la que estamos reclamándola por lo tanto hasta ahí

que no tenemos modelo y que estamos en las antípodas de lo que nos dice la sociedad

o sea que toda la sociedad nosotros no estamos en las antípodas de lo que dice toda la sociedad

de lo que dice usted y gracias a dios estamos muchas veces en las antípodas de lo que usted

bigarren puntua derecho civil foral vasco